arratsalde on legebiltzarkideok buenas tardes a todos gran éxito de audiencia venimos de nuevo

el acceso a los servicios sanitarios para todas las personas que residen en euskadi con independencia de su renta

identidad sexual enfermedad o cualquier otra circunstancia personal o social es decir venimos a intentar garantizar el derecho

establecido en la ley general de sanidad desde mil novecientos ochenta y seis porque la situación administrativa de quien requiere el servicio público de sanidad

en la ley general está avalada expresamente por el tribunal constitucional que ahora hace un año y a raíz de las alegaciones presentadas al respecto por el gobierno de patxi lópez determinó que se trata de una cuestión de derechos humanos

que además la no atención regulada a los inmigrantes en situación administrativa irregular repercutiría en la salud

porque impide las necesarias prevenciones que son consideradas

en la atención pública sanitaria como hoy todos coincidiremos en esta cámara contamos con una voluntad mayoritaria por parte de los ciudadanos vascos además contamos con la resolución del constitucional que da apoyo jurídico a esta demanda sin embargo la orden dictada en julio por el consejero excluye de ese principio general a quienes llevan empadronados en euskadi menos de un año

se justifica esta decisión en que el decreto alternativo que hizo el gobierno socialista en junio del dos mil doce a los recortes impuestos por rajoy ya establecía ese límite pero como décimos con posterioridad a este decreto

incluso más amplio que luego fue avalado por el constitucional por eso registramos esta proposición en su día aunque antes de someterla a debate en esta cámara hemos preguntado y quisimos escuchar al gobierno y a las asociaciones que trabajan con los inmigrantes al consejero le preguntamos en un pleno hace dos meses y no nos respondió más que su habitual referencia bien intencionada a que se trabaja con las personas

después compareció en sanidad el directo de aseguramiento que explicó que se había dispuesto

en situación administrativa irregular sin descartar que si hubiesen producido facturaciones por las atenciones prestadas ni cobros a estos inmigrantes pedimos concreciones por escrito y hace unos días

pero no ha habido ninguna concreción ni datos al respecto sobre precisamente este tipo de atenciones y las facturaciones correspondientes

sobre el recurso del abogado del estado contra la orden de atender a irregulares en este caso se nos ha remitido el expediente del procedimiento abierto en el tribunal superior pero no el contenido que argumento el gobierno central asimismo hemos tenido ocasión

quien se ocupa de canalizar las demandas que surgen en esta materia y reconocemos el trabajo de este colectivo que incluye

refugiado colectivo que va a ser galardonado por el propio gobierno por su defensa de los derechos humanos

universalidad de la atención nos recordó que el aseguramiento no está ligado a la cotización de la seguridad social presentó la demanda de que

y que se elimine el requisito del año de empadronamiento para acceder a la tarjeta individual

que no es el primer problema con el que se enfrenta la expansión del derecho a la protección de la salud de hecho el primer lugar en españa donde se implantó la tarjeta sanitaria fue euskadi se hizo de la mano de un consejero socialista josé manuel freire en mil novecientos ochenta y ocho

tampoco estuvo exenta de conflicto pero se hizo y se hizo acudiendo a la ley general de sanidad y a la capacidad competencial

y sobre todo gracias a una voluntad política compartida especialmente por los socialistas y el partido nacionalista vasco partidos que entonces formaban un gobierno de coalición

venimos a pedir que se complete desde la seguridad jurídica y la plena convicción y voluntad política que la situación administrativa

y asignar médicos específicos para los inmigrantes muestra buena voluntad pero no garantiza derechos es hacer que estas personas accedan a un servicio público por una puerta distinta a la del resto de los ciudadanos residentes en euskadi y eso es estigmatizar a las personas

no conceder una tarjeta aunque sea provisional a quienes llevan menos de un año dificulta un eventual tratamiento farmacológico así como la atención al especialista

siempre que este no sea urgente porque nosotros respaldamos en su momento y ahora mismo también de nuevo la previsión que se hace

en torno a los inmigrantes irregulares pero su garantía la garantía del tratamiento y de la compensación farmacológica tiene que tener forma de tarjeta individual sanitaria

y como al resto de los ciudadanos tener un seguimiento de sus procesos de enfermedad en definitiva le pedimos al gobierno

como ha hecho en el tema del repago sanitario que no vuelva a oponerse a una medida que garantiza un derecho y que no ponga de excusa el recurso del abogado del estado tenemos larga experiencia de implantación de un servicio público modélico y garantista también experiencia de dificultades habidas en el camino

con esa experiencia con el criterio del tribunal constitucional y con la voluntad política podemos hacer posible que quienes tienen una situación administrativa irregular

al derecho a la protección de la salud y el acceso a los servicios sanitarios hemos firmado un acuerdo transaccional con el grupo upyd porque creemos que compartiendo un mismo análisis de la situación y coincidiendo en las medidas que son necesarias tomar la incorporación

que ha mostrado ha permitido alcanzar esta enmienda de transacción

las aportaciones de eh bildu que han contribuido a conformar el texto de esta enmienda de transacción y que de este modo han contribuido a completar y mejorar la iniciativa original

compareció en la comisión de salud a petición de euskal herria bildu para que explicase el desarrollo de la orden de este año que articula el decreto ciento catorce en esa misma comisión tuvimos conocimiento del recurso que ha interpuesto la abogacía del estado contra dicha orden y aparte de esto último no sacamos muchas cosas más en claro

por tanto seguimos teniendo las mismas dudas y las mismas preocupaciones que hace un mes nos preocupa que se hayan derivado o se deriven a urgencias a las personas que no poseen la tis hecho que por otra parte no contribuye a cambiar la percepción racista

que parte de esta sociedad tiene hacia este colectivo nos preocupa

tengan que pagar el cien por ciento de los medicamentos el gobierno no ha conseguido aclararnos después de mucho preguntar

una factura por el servicio que se les presta en urgencias en alguna ocasión nos han dicho que sí en otras que no

pero la verdad es que hemos escuchado hasta en dos comparecencias diferentes que ciertamente hay facturas remitidas y

y seguimos debatiendo los mismos términos porque la situación no ha cambiado y creemos que el gobierno no ha dado ni un solo paso para garantizar el derecho a la atención

por eso tenemos el convencimiento de que es el momento de dejar de poner excusas para pasar a los hechos badakigu estatuaren abokatuak errekurtsoa ezarri duela

talde guztiak y en cuanto a las otras dos enmiendas que quedan que son las del grupo nacionalista vasco

pero sin ninguna concreción ni la enmienda a la totalidad del partido popular imposible desde luego llegar a un acuerdo con su enmienda viendo su posición y la nuestra la verdad es que nos preocupa sobre todo la última frase cuando dice

con una gestión eficiente de los recursos asistenciales con el fin de no poner en riesgo

espero de verdad que hayan querido decir otra cosa diferente a la que nosotros entendemos eskerrik asko eskerrik asko blanco

muchas gracias buenas tardes el grupo socialistas vascos proponía inicialmente instar al gobierno vasco

en los términos previstos por el decreto de junio de dos mil doce y avalados por el tribunal constitucional de forma que ninguna persona que reside en euskadi quede sin asistencia primaria inicialmente nos parecía correcta esta iniciativa pero

enmienda de totalidad con el objetivo de que se garantice la asistencia sanitaria completa a todas las personas residentes en la comunidad autónoma vasca independientemente de cuál sea su situación legal debo reconocer que nuestra enmienda presentada incorrecta no habría que proponer la modificación de la orden del actual gobierno vasco sino que lo que habría que hacer sería modificar el decreto del gobierno

técnico pero en todo caso sí que nuestra intención era garantizar como se dice ahí la asistencia sanitaria completa a todas las personas residentes en euskadi

su situación legal para que quede claro compartimos la recomendación del ararteko que se permita el acceso a la asistencia sanitaria de las personas necesitadas que no puedan hacerlo en función de la

empadronamiento creo que ha quedado esto claro una vez que nuestro grupo ha firmado la enmienda de transacción con el grupo socialista todo esto comienza otra vez con una normativa injusta del actual gobierno de españa en este caso todo comienza con el real decreto del gobierno el real decreto dieciséis barra dos mil doce llamado para la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones lo cierto es que el gobierno de españa a través de la ministra de sanidad servicios sociales e igualdad ha venido enfatizando permanentemente la publicación de este real decreto

las siguientes necesidades necesidad urgente de garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud necesidad de clarificar los titulares del derecho a la protección de la salud a través de una normativa estatal necesidad de adaptar la normativa española a la legislación europea para evitar el abuso

necesidad de garantizar un igual acceso a prestaciones sanitarias en función de la comunidad autónoma en la que se resida mediante la modificación de la cartera común básica

y una tarjeta sanitaria común interoperable y necesidad de eliminar duplicidades y trabas burocráticas para que los profesionales sanitarios puedan desarrollar su carrera

nacional sin impedimentos de movilidad digamos que estos eran los argumentos que ha venido exponiendo la ministra durante el tiempo en que se tramitó este

sin embargo lo cierto es que la publicación de este real decreto ley no soluciona muchas de las necesidades esgrimidas para su elaboración la realidad de los hechos más allá de la propaganda del partido popular es que este real decreto trabas burocráticas este real decreto no garantiza un igual acceso a prestaciones sanitarias en función de la comunidad autónoma en la que se resida este real decreto ley no aumenta la cohesión del sistema nacional de salud

no ha conseguido frenar el deterioro de los servicios de sanidad en diferentes comunidades autónomas podemos echar la vista a lo que ha venido ocurriendo en la comunidad autónoma de madrid

de los dependientes como se prometió en un inicio y desde luego el real decreto ley del gobierno de españa no universaliza la sanidad como ha venido afirmando la ministra de sanidad si no que hace que la sanidad sea menos universal esta es la realidad quedan cubiertos

o estén cubiertos por esta por parentesco familiar con un asegurado toda persona mayor de veintiséis años que no haya cotizado y que no esté cubierto por sus progenitores quedaría fuera

incluso en casos en el que el tratamiento de sus enfermedades

pudiera suponer riesgos para la salud pública en conclusión el real decreto ley hace que la sanidad en españa sea menos gratuita

y menos universal upyd se posicionó en contra del real decreto del gobierno de españa upyd además ha presentado

sanitaria upyd votó en contra obviamente de este real decreto ley y además hemos realizado preguntas en relación al cobro por la asistencia a inmigrantes indocumentados

asturias murcia o en la asamblea de madrid por lo tanto con la aprobación del real decreto ley dieciséis barra dos mil doce

la atención sanitaria de las personas extranjeras en el sistema nacional de salud se ha limitado a quienes se encuentran en situación administrativa irregular y posteriormente

reconoció a estas personas su derecho a la asistencia sanitaria previo cumplimiento de determinados requisitos el decreto del gobierno lópez supuso que quienes tienen restringido el acceso a la asistencia sanitaria en el sistema nacional de salud en el ámbito de euskadi sin embargo la limitación de un año dejaba sin derecho a asistencia a las personas que no cumplieran el requisito de empadronamiento previo durante y nosotros queremos que se elimine el requisito de empadronamiento previo posteriormente llegó el auto del tribunal constitucional de diciembre de dos mil doce al justificar el levantamiento de la suspensión de la vigencia del decreto ciento catorce barra dos mil doce

de las personas a quienes afectan las medidas impugnadas por el estado así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad el tribunal constitucional hacía suyos los argumentos del gobierno vasco considerándolos vinculados a la defensa de bienes constitucionales particularmente sensibles

por la mera consideración de un ahorro económico el derecho a la salud ligado al acceso a las prestaciones sanitarias es un derecho humano fundamental y universal que debe aplicarse a todas las categoría

este derecho humano fundamental en cualquier lugar y también aquí en euskadi la orden del consejero de salud del actual gobierno supuso un paso atrás esta orden obvia la situación provisional euskadi excluye del derecho a la salud universal y gratuita a quienes lleven empadronados menos de un año salvo determinadas excepciones y las urgencias

estamos de acuerdo con la recomendación realizada por el ararteko que se revise el límite de un año de empadronamiento establecido en el decreto ciento catorce barra dos mil doce

de manera que sea posible el acceso efectivo a la asistencia sanitaria de las personas que no tienen la condición de aseguradas ni beneficiarias del sistema nacional de salud es por esto que nosotros hemos firmado la enmienda de transacción que hemos firmado con el grupo se trata de instar al gobierno vasco a modificar toda la normativa en vigor que en el momento actual impide el acceso a todas las personas a recibir atención sanitaria universal se trata de desarrollar la normativa necesaria para garantizar la asistencia sanitaria tanto primaria como especializada

jurídico administrativa respetando los criterios de equidad y universalidad tomando como ejemplo según se dice en la transaccional las fórmulas adoptadas en navarra

una tarjeta individual sanitaria que garantice su atención sanitaria universal creo que esto es todo lo que desde aquí podemos hacer

para poner freno a los recortes permanentes impulsados por el gobierno de españa también en el campo sanitario queremos defender

fundamental como es el derecho a la salud y por lo tanto hemos firmado esta transaccional con el grupo socialista gracias eskerrik asko maneiro jauna

haber visto un poquito más de rigor al menos o por lo menos de sentido común ya no voy a pedir

que igual no tienen muchos conocimientos de derecho pero me gustaría ver a partidos que se definen como de ámbito nacional como pueden ser el partido

y upyd porque no ha habido una resolución sobre el fondo del asunto en relación a este tema a este conflicto de competencias el decreto del gobierno vasco está impugnado

y de otros no de otros no se han levantado la suspensión todos los que tiene que ver con el copago farmacéutico o sea quiero ver al partido socialista y a upyd partidos que se defienden de ámbito

lo proclaman por activa y por pasiva especialmente alguno de ellos

el tribunal constitucional decide que hay conflicto de competencias y tiene que primar el decreto promulgado por el gobierno central me va a gustar ver y recordar las manifestaciones

a la desobediencia y a no cumplir la resolución del tribunal constitucional porque me sorprendería sobre todo de upyd me sorprendería

pero de upyd me sorprendería bastante vista esta iniciativa el partido socialista presenta alguna contradicción a la que luego al final de mi intervención me referiré y sin duda la situación

ha dejado en evidencia a las deficiencias y carencias del sistema nacional de salud eta ongizate sisteman aurrera egin nahi badugu ezinbestekoa da

neurriak bideratzea beti herritarren osasun babesa mantenduz y por esa razón se aprueba el real decreto ley

de dos mil doce de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad

porque precisamente se garantiza que haya prestaciones comunes en el ámbito nacional entre las diferentes comunidades autónomas entre otras

esas diferencias a las que usted hace en su referencia en su discurso de forma recurrente por lo tanto

en esta tribuna es total y ya veremos encima si el pronunciamiento del tribunal constitucional

es a favor del conflicto de competencia si tiene que primar el decreto del gobierno central no sé si entonces usted

las medidas que se contemplan garantizan el actual modelo sanitario

para el acceso a la asistencia sanitaria invitando incertidumbres inseguridades y abusos

que cualquier persona sin concurrir los requisitos legales y por el mero hecho de estar empadronado en nuestro país tuviese derecho a la asistencia sanitaria

la tarjeta sanitaria y estamos hablando de asistencia sanitaria al conferir porque aquí la tarjeta sanitaria sigue siendo

es el derecho a la tarjeta sanitaria que no solo confiere derechos en el presente sino en el futuro digo que entre otras cosas

solo a sacarse la tarjeta sanitaria volvieran a sus países de origen por ejemplo se operasen y la sanidad española se hiciera cargo de esa operación y de la posible atención futura que esas personas podían hacer en las sanidad en sus países de origen incluso en la de sus familiares el sistema sanitario español estaba por otra parte

la asistencia sanitaria de personas que ya la tenían cubierta en sus países de origen esto fue posible estos abusos se produjeron por no

porque no se traspuso debidamente es que esto es así señorías la normativa comunitaria correspondiente y esta dejación o pasividad del anterior gobierno socialista

y abusos como evidencia que durante el año dos mil nueve según un informe del tribunal de cuentas nuestro país dejara de facturar

a otros países por la asistencia sanitaria a más de setecientos mil ciudadanos

se evita el uso la existencia de fraude en la prestación de servicios sanitarios y se facturará de manera rápida y directa a los países de origen

como sucede cuando cualquiera de nosotros vamos a otro país de la unión europea es una reforma que garantiza la universalidad y evita el turismo sanitario ninguna persona que lo necesite va a quedar desatendida sea española o de otra nacionalidad

es el acceso a la tarjeta sanitaria pero se evita que por lagunas administrativas puedan beneficiarse de forma gratuita de los servicios sanitarios españoles de los sistemas de salud los ciudadanos de otras nacionalidades que no tengan residencia en españa ya porque sean turistas ya porque residen de forma irregular en españa no van a quedar desatendidos por lo tanto no nos engañen y no intenten generar una alarma

a la realidad en cuanto a los turistas comunitarios se facturará la asistencia a su país a través de la tarjeta sanitaria europea

por la no trasposición de esa directiva adecuadamente con el gobierno socialista como decía como nos exigen a los españoles como cuando vamos a cualquier país europeo y si no la tienen o son extracomunitarios se hará a través de sus seguros de viajes o aplicando lo que establecen los convenios bilaterales

siempre asistencia sanitaria en casos de urgencia por enfermedad o accidente hasta la situación de alta médica

mucho más generosa que ninguno de los países de la unión europea la asistencia sanitaria a todos los menores de edad en todos los casos y en igualdad de condiciones que los españoles ningún otro país de la unión europea

en situación irregular ninguno y si no les insto a que en esta tribuna me digan alguno de ellos

a través de convenios o programas de prevención y control de enfermedades por lo tanto no creen alarmas innecesarias es que con anterioridad al real decreto ley promulgado por el gobierno central empadronamiento en un municipio español bastaba para reconocer el derecho a la asistencia sanitaria generando esos derechos futuros referencia a los que he hecho referencia y la regulación la nueva regulación ha puesto fin al cúmulo de irregularidades en relación

que esta era una situación que tampoco estaba solucionado no se tendrán que declarar personas sin recursos como pasaba antes también con el gobierno del partido socialista

soluciones a través de convenios especiales también podrán ser titulares de la tarjeta sanitaria los menores de veintiséis años y las divorciadas

ha levantado la suspensión de algunos de los artículos del decreto del gobierno vasco decreto ciento catorce barra dos mil doce del veintiséis de junio

no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto por lo tanto señora roncal cuando usted dice que ha avalado el decreto del gobierno vasco no lo ha avalado

no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto no ha entrado en el fondo del asunto y usted lo sabe y por cierto no levanto la suspensión de todos los artículos que se referían al copago y por eso usted no dice que avaló dicho decreto por lo tanto si a usted le vale el argumento para una cosa también le tiene que valer para otra y haciendo referencia a la enmienda de transacción

que alcanzan los tres partidos entiendo que la enmienda de transacción vaya firmada por upyd y por el partido socialista pero que también obviamente lo apoya eh bildu desde luego

rechazar recortes sociales desde luego este decreto ley lo que ha intentado y ha hecho a la vista de los datos es poner orden donde había desorden

que las situaciones sean regulares donde había irregularidades y que no haya abusos donde había abusos porque no se traspuso debidamente una normativa comunitaria

a los ciudadanos europeos que venían aquí como se nos exige o se nos exigía a nosotros cuando íbamos a otros países de la unión europea

acceso a la tarjeta sanitaria que no solo da asistencia sanitaria en el presente sino también en el futuro y por lo tanto esas personas iban a sus países de origen y ya

iba a cargo del sistema sanitario español por lo tanto eso es lo que ha hecho el real decreto ley eso es lo que ha hecho el real decreto ley

el partido socialista pues no sé a qué está jugando porque desde luego ustedes en el decreto que promulgaron el que está recurrido

y hoy aquí en esta iniciativa nos habla de que independientemente de la situación jurídica administrativa se garantice la asistencia sanitaria o sea ustedes cuando estaban gobernando pusieron el requisito de un año de empadronamiento

y ahora ustedes vienen aquí y nos dicen que ni requisito de un año de empadronamiento ni ninguno pues ustedes sabrán pero desde luego para el partido popular eso no es serio no es riguroso y desde luego lo que no es en absoluto es coherencia de un partido
que ha tenido responsabilidades de gobierno en una comunidad autónoma eskerrik asko garrido andrea

usted coincide conmigo en que el real decreto

nuestras competencias y recorta derechos sociales que estamos en contra usemos nuestra competencia usemos nuestro gobierno para defender los derechos

pongámonos todos de acuerdo al menos todos los que estamos de acuerdo en rechazar los recortes sociales y en defender nuestro autogobierno pongámonos de acuerdo para efectivamente dar un paso más adelante y continuar con todos los instrumentos jurídicos que nos da nuestro

para rechazar de plano el decreto dieciséis barra dos mil doce es verdad que el gobierno socialista previó en el decreto ciento catorce el año de empadronamiento pero también es verdad y no se ha dicho aquí

temporales cada tres meses se renovaban y nunca ni un solo inmigrante durante este periodo hasta del dos mil trece tuvo rechazo de alguna asistencia sanitaria ni factura por la atención sanitaria sin embargo es verdad que no se han dado demasiados datos pero alguno se ha dado se ha facturado por asistencias sanitarias

es verdad que dicen que no se ha cobrado pero ahí queda la factura no la han retirado y cuando

se le facturará se le cobrará se pretenderá cobrar y es contra eso contra lo que estamos en desacuerdo no estamos de acuerdo en ni facturar a los inmigrantes para en el futuro

creemos que como el resto de los ciudadanos tengan acceso libre y universal a los servicios sanitarios

con todo cariño el turismo sanitario también lo rechazamos también lo rechazamos

del listado de derecho a quienes por múltiples circunstancias necesitan hacer posible su derecho a la protección de la salud también tengo que decirle que tiene usted un argumento recurrente y que les gusta mucho hablar

en las ayudas o en la sanidad es decir las corruptelas y fraudes de los más vulnerables

bastante más importantes y luego decirle que aquí no hay efecto llamada nadie cruza el atlántico ni esquiva las concertinas de las vallas de melilla para operarse del menisco señora garrido el efecto llamada que pueda existir sería de las comunidades autónomas vecinas

a quien por haber sido abandonado a la prestación de la asistencia sanitaria gracias al decreto de rajoy tiene que acudir a nuestra comunidad autónoma que es más comprensiva y que respeta más los derechos universales el responsable en ese caso es el gobierno de rajoy

está sucediendo eso y me extraña que usted en su iniciativa después de haber tenido en su mano el informe del gobierno haga una enmienda diciendo

usted cree que puede poner en riesgo la sostenibilidad del sistema atender

ciento ochenta y cinco en gipuzkoa y trescientos noventa

esto no es por la sostenibilidad del sistema ustedes saben a qué va

que ustedes quieren poner en marcha privatizando y eliminando del sistema a todos aquellos

bai eskerrik asko berriro señora garrido la tengo que felicitar de verdad que la admiro

y voy a parafrasear a su compañera de grupo evidentemente ustedes y nosotros estamos en dos universos paralelos en cuanto a la enmienda de transacción que se ha firmado evidentemente vamos a votar a favor pero hemos tenido que hacer encaje de bolillos

para al final conseguir lo que vamos a aprobar esta tarde lo que vamos a aprobar porque nos importa el contenido

impide el acceso a las personas a recibir atención sanitaria universal

totalmente de acuerdo algunos grupos tienen dificultades para firmar con nosotros y como tienen dificultades como digo tenemos que hacer encaje de bolillos para que nuestra propuesta al final se pueda aprobar pero nuestro grupo no tiene ningún inconveniente

porque lo que nos importa como digo es el contenido y lo que aquí se va a aprobar nuestra postura y lo que nosotros hacemos por conseguir lo que hoy se va a conseguir aquí ustedes no lo hacen y como digo

una enmienda de transacción que parecía fácil porque al final ha sido la misma posición que hemos tenido en las comisiones informativas pero no ha sido posible orduan

sí gracias presidenta la verdad es que yo no he tenido ninguna dificultad en firmar esta transaccional

únicamente he hablado con la señora roncal nos hemos puesto de acuerdo en el contenido de la transaccional y yo la he firmado por lo tanto no he tenido que hacer

y ni he tenido tampoco ninguna dificultad en llegar a este acuerdo para pedir al gobierno vasco no al olentzero lo que ahí se propone porque me parece que es algo de justicia

garrido dice que no tenemos sentido común no sé si no tenemos sentido común yo creo que ustedes no tienen ni sentido común

especialmente contra los sectores más débiles de la sociedad ni tienen tampoco en la aplicación de las diferentes políticas de todo tipo que están aplicando desde el gobierno de españa puede ser que no tengamos sentido común a mí en todo caso esta transaccional que hemos firmado me parece de total sentido común me parece justa me parece y por eso la hemos firmado quizás no tengamos sentido común ustedes no tienen piedad en la aplicación de las políticas de recortes sociales que llevan impulsando desde que llegaron al gobierno esta es la realidad

y eleva más el tono cuanto más imposible es defender determinadas iniciativas por mucho que eleve el tono lo cierto es que no tiene más razón

hemos llegado a un buen acuerdo yo lo he dicho al principio este real decreto ley planteaba la necesidad urgente de garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud

pretendía o decía que pretendía garantizar la necesidad de clarificar los titulares del derecho a la protección de la salud

hablaba de la necesidad de adaptar la normativa española a la legislación europea para evitar el abuso del turismo sanitario se hablaba de eliminar trabas

se hablaba de defender una política nacional común para todo el territorio se hablaba de todo esto ciertamente pero lo cierto es que este real decreto ley se tramitó de ese modo se tramitó como real decreto ley y por lo tanto no se pudieron presentar ni enmiendas ni se pudo

ni se pudo votar a favor de alguna de las cuestiones que se planteaban en ese real decreto no se pudo hacer un debate serio sobre las diferentes cuestiones que en ese real decreto se planteaban algunas de ellas ciertamente interesantes

al turismo sanitario definir una cartera básica común o la supresión de duplicidades entre otras la mayoría

y entre ellos de lo que estamos hablando hoy aquí la limitación de acceso a la atención sanitaria para determinadas personas cosa a la que nos oponemos contundentemente

hablando en el punto de hoy no de otras cuestiones no de ese real decreto en su globalidad sino efectivamente a la atención sanitaria de los inmigrantes este real decreto hace la sanidad menos universal

la atención sanitaria de las personas que se encuentran en situación administrativa

lo compartimos en absoluto siempre pone la excusa de que no hay dinero suficiente o de que hay que mantener la sostenibilidad del sistema

el sistema se va a venir abajo de tanto querer mantenerlo

nosotros nos oponemos por lo tanto contundentemente qué era lo que decía el auto el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas afectadas por las medidas impugnadas así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad

que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser entendemos que se justifica el levantamiento de la suspensión de la vigencia de los preceptos referidos a la ampliación del ámbito subjetivo del derecho a acceder a la asistencia pública y gratuita esto es lo que nosotros estamos defendiendo el derecho a la salud es un derecho humano fundamental

que debe aplicarse a todas las categorías de la población esto es lo que nosotros defendemos por lo tanto sí partido nacional partido

partido que defiende la cohesión del sistema nacional de salud que defiende la igualdad que defiende una cartera básica común

pero que por encima de todo señora garrido defendemos el derecho a la salud como un derecho fundamental y como un derecho universal esto por lo tanto por encima de todo defender derechos fundamentales

de manera absolutamente coherente con nuestra trayectoria en esa enmienda transaccional gracias

de racismo como ha dicho la señora blanco o de piedad como ha dicho

de garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud un sistema que tenía una deuda de dieciséis mil millónes de euros cuando llegó el gobierno del partido popular se trata de arbitrar todas aquellas medidas que permitan precisamente que el sistema sea sostenible porque por el camino que íbamos desde luego lo que iba a ser todo menos sostenible

sigue siendo universal y sigue siendo gratuita no hay en absoluto cambio de modelo por lo tanto no hagan demagogia y no generen alarma donde no la hay y desde luego el que ha tenido que hacer encaje de bolillos le doy la razón señora blanco por una vez

esta enmienda de transacción cuando hay un decreto

no hay un pronunciamiento definitivo del tribunal constitucional sobre el fondo del asunto cuando ese decreto establecía un plazo de empadronamiento de un año para la atención sanitaria cuando el partido socialista y upyd hoy firman aquí

establezca ese plazo de un año y cuando no hay un pronunciamiento del tribunal constitucional no entiendo que partidos que se definen de ámbito nacional

esta enmienda del partido socialista pues ya una se cree casi todo de la deriva además que lleva últimamente pero de upyd

cuando no ha habido un pronunciamiento del tribunal constitucional que esté instando a este gobierno cuando hay un conflicto de competencias

pues qué va a hacer usted no sabemos lo que hará el tribunal constitucional desde luego el partido popular respetará

porque tiene una enmienda firmada para que este gobierno haga otro decreto

presume tanto de ser un partido de ámbito nacional puede llegar a firmar un texto de estas

he dicho una cosa es la asistencia sanitaria y otra cosa es la tarjeta sanitaria

es decir aquí venían ciudadanos venían ciudadanos porque ya vienen menos lógicamente porque se ha puesto orden venían ciudadanos

precisamente porque confiere derechos a futuro se iban a su país de origen se operaban las veces que fuera

aquí venían turistas y como no se traspuso debidamente durante el gobierno del partido socialista una directiva comunitaria cuando venían turistas aquí

sí sí sí estamos también hablando de eso porque todo eso ha llevado a una deuda de dieciséis mil millónes de euros con el gobierno del señor zapatero sí hablamos de eso

sí sí sí ha costado mil millónes de euros y setecientos mil ciudadanos que no se sacaron la tarjeta sanitaria isildu mesedez porque no se traspuso debidamente la tarjeta cuando ciudadanos

y aquí pasaba que estábamos pagando la tarjeta sanitaria a ciudadanos europeos que la tenían pagada en su país

y mire señora roncal desde luego ni rigor ni coherencia

porque le voy a leer una cosa que me imagino que la conocerá en relación a las personas extranjeras que solicitan asistencia sanitaria recordaba

los extranjeros que necesitan visado para entrar en la ue deben entrar

los extranjeros que no necesitan visado tienen que acreditar que llevan noventa días por lo tanto no se debe gestionar ni tramitar ninguna tarjeta sanitaria ni la tarjeta provisional de asistencia sanitaria ningún extranjero en situación de estancia

de tiempo no superior a noventa días aún estando empadronado aun estando empadronado repito se puede acoger a la asistencia sanitaria

firma esta es una circular que se repartió en todos los centros de salud respuesta a la parlamentaria nerea antía

no es más restrictiva de lo que según

incluso el tribunal constitucional avaló en su día la citada orden esta orden respeta literalmente los requisitos exigidos en el decreto ciento catorce y también

pero el auto en ningún momento alude a que se puedan modificar los requisitos que el propio decreto

se ciñe a los requisitos que están recogidos en el decreto

a los inmigrantes en situación irregular sin exigir los requisitos eso es cierto

en esos meses estaba suspendido en su aplicación hasta el trece de diciembre

entonces hasta entonces no eran aplicables estos requisitos o sea era una situación jurídica completamente diferente

después del trece de diciembre nosotros desde luego no dudamos cuando afirma

la expedición de tarjetas provisionales lo prevería pero no se plasmó en ningún sitio ni siquiera en el propio decreto ciento catorce no aparece en ningún sitio la orden del consejero de julio no contempla esa previsión

uno de los tres requisitos que contempla el decreto

una cosa completamente diferente el señor maneiro ha dicho que euskadi excluye por primera vez del derecho a la salud universal y gratuita

menos de un año pero es que esto no es así es que esto en el propio decreto del gobierno anterior

lo haya hecho es que ya estaba así entonces lo que no entendemos es al final

por qué no fueron nueve por qué no fueron seis como ha hecho la diputación de gipuzkoa

algún día nos lo explicarán por qué no tres meses o directamente se le concede a todo el que lo solicite

por lo tanto el departamento de salud a pesar de toda esta situación ha dictado instrucciones

para que sean consideradas objeto de tratamiento las enfermedades infecto contagiosas

supongan un riesgo para la salud pública y por otro sea asignado un médico de cabecera a las personas que no cumplen el requisito temporal de un año de empadronamiento

pero cosas se están haciendo respecto

de que el gobierno vasco debería publicar un nuevo decreto el miedo que tenemos es que si se toma la decisión de publicar un nuevo decreto ya lo hemos visto recientemente es muy probable que el gobierno central vuelva a impugnarlo ante el tribunal constitucional lo que provocaría la suspensión automática del decreto ciento catorce

un vacío legal y bueno

arratsalde on guztioi siento muchísimo tener que volver a esta tribuna

al recorte presupuestario del gobierno vasco en materia de cooperación y a solicitar el cumplimiento del mandato parlamentario

sobre el sentido de estas sesiones plenarias si cuando toda la oposición de esta cámara aprueba una propuesta que es ignorada absolutamente por el gobierno vasco por tanto voy a reiterar los argumentos utilizados

en los últimos treinta años la cooperación vasca descentralizada ha sido para muchos pueblos

un signo de compromiso y solidaridad en el proceso de transformación social ciertamente la solidaridad internacionalista y los procesos de transformación de los últimos años

y tenían en cuenta la responsabilidad común en la defensa de los derechos humanos teniendo como base la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres nazioarteko lankidetzaz

desde euskal herria bildu partimos de la idea de ciudadanía universal y por tanto la universalidad de los derechos humanos y no se puede limitar los derechos para mantener los privilegios de los que han generado la crisis

suponiendo un desmantelamiento paulatino pero acelerado de la cooperación vasca

un retroceso de once años la política de cooperación es una política social y por tanto el recorte que de ahí se realice no merece otro reconocimiento que el de recorte social

la cooperación para el desarrollo constituye una política en sí misma no se trata de un conjunto de medidas o actividades puntuales ligadas al asistencialismo a la caridad

la internacionalización de las empresas o la obtención de recursos económicos en relación a los fondos otorgados al contrario se trata de una política de carácter permanente y estable fruto de la voluntad política y solidaridad internacional con justicia social

tiene una traducción humana una clara repercusión en materia de educación sanidad equidad de género participación en los asuntos públicos acceso al agua potable y sistemas de saneamiento lucha contra el hambre y sus causas en miles de personas que viven en situación de extrema pobreza y desigualdad en los países empobrecidos

atajando sus causas y paliando sus consecuencias en las poblaciones más vulnerables

asimismo tal y como indica la propia asamblea de trabajadoras y trabajadores del sector de la cooperación al desarrollo muchas personas están perdiendo sus puestos de trabajo

los y las trabajadoras del sector están sufriendo un continuo deterioro en sus condiciones laborales en algunos casos bastante precarias

en momentos como estos en los que la crisis civilizatoria que padecemos azota con mayor virulencia

han caracterizado la cooperación vasca para poder continuar con su trayectoria por la lucha por un mundo más justo efectivamente es fundamental

ya que afecta fundamentalmente a los colectivos más vulnerables como las mujeres las niñas y los niños politikak lantzerako orduan pertsonak izan behar dute gure erabateko

en muy diferentes países y con muy diferentes agentes sociales y políticos que definen una experiencia de treinta años de relaciones internacionales

cogiendo fuerza mensajes peligrosos ante la crisis y sus consecuencias mensajes que se traducen como primero los de aquí la cooperación es prescindible no es un derecho mensajes

es una obligación ética y política en el cumplimiento de los derechos humanos todo es posible con unos presupuestos sociales y solidarios todo lo contrario a lo que nos plantea el partido nacionalista vasco con su propuesta presupuestaria con el apoyo ahora del partido algo que no sé porque me ha sorprendido viniendo de formaciones políticas a las órdenes del capital es imprescindible una vez más volver a destacar el cuatro de julio de dos mil doce

recursos estables y previsibles de financiación para el desarrollo sin renunciar en un futuro próximo

y ni siquiera este compromiso de mantener recursos estables y permanentes de financiación para el desarrollo se cumple elkartasun internazionalistaren kontrako eraso honen aurrean

en defensa de la equidad de genero y el empoderamiento de las mujeres como elementos imprescindibles de transformación social sin duda el impacto del recorte presupuestario en cooperación

la desaparición de campañas de lucha contra la violencia machista femicidios paralización de procesos de educación y sanidad para las mujeres y las niñas

procesos de lucha contra la pobreza y autonomía económica de las mujeres entre otras como muchas otras esto es una cuestión de voluntad política que atañe a los partidos políticos a las instituciones y a la sociedad para generar

políticas que generen recursos para el reparto y la redistribución de la riqueza que combatan las desigualdades generadas por la globalización neoliberal es por lo que desde euskal herria bildu hemos registrado esta proposición no de ley para instar al gobierno vasco por una parte a que cumpla un mandato parlamentario de veinte de junio de dos mil trece ya que destine en su propuesta presupuestaria para el periodo de dos mil catorce al menos

manifestando mi indignación absoluta por la actitud del partido socialista un partido que se define de izquierdas

la cooperación y fondos previsibles de financiación pero que ni siquiera podría votar una enmienda a la totalidad que ellos mismos han hecho

si a mí me toca esa papeleta yo por dignidad no lo habría hecho sinceramente

un mantenimiento mínimo de financiación para la cooperación al desarrollo y ahora con quienes criticaban firman una transaccional
por una irrisoria cantidad es absolutamente vergonzoso pero continuaré en mi réplica eskerrik asko eskerrik asko urrea

buenas tardes gracias señora presidenta señorías lehendakari bien brevemente puesto que es un debate

señora urrea en el debate presupuestario cuando

finalmente es ese debate presupuestario si hay algún margen de actuación si algo podemos hacer si algo podemos mejorar

reaccionar y analizar la actitud del gobierno en esta materia nosotros planteamos una iniciativa allá por junio

en esta cámara en un pleno de control una interpelación al lehendakari y nosotros

para confrontar nosotros no lo vamos a hacer no es un tema para confrontar en aquella iniciativa también le dije

periodo de dificultades pero que el gobierno tenía que hacer un esfuerzo

de la proposición no de ley a la que usted ha aludido y que todos votamos algunos votamos y que salió aprobada por mayoría pero vuelvo a decir

mi grupo no lo va a coger como un elemento de confrontación de momento ahora vamos a ver si el gobierno se obstina

desde luego le pediremos cuentas y le exigiremos

que pueda ser de otra manera en relación con cambios legislativos pero vuelvo a decir mi grupo no lo piensa hacer hoy no piensa confrontar seguiremos exigiendo al gobierno vasco

en una cooperación al desarrollo de la que y eso sí que no queremos perder el país vasco siempre ha sido ejemplar bueno queremos seguir siéndolo por eso mismo

o en actitudes excesivamente drásticas

para hablar de esta cuestión para ver qué margen de actuación tiene el gobierno qué margen de actuación

el partido socialista y el partido nacionalista vasco nosotros en este debate hoy nos vamos a abstener en todas las iniciativas vamos a ver vuelvo a repetir la disposición del gobierno en el debate de las enmiendas parciales y en el siguiente periodo de sesiones seguiremos exigiendo y pidiendo cuentas o valoraremos

se va a demostrar en el debate presupuestario y en la puesta en marcha de ese presupuesto en el año dos mil catorce nuestra enmienda de totalidad era más después de haber debatido este año en junio sobre este tema era más testimonial que otra cosa se sumaba al debate presupuestario de alguna manera en el debate presupuestario ya tenemos alguna enmienda de adición

pero nosotros incluíamos una adición más nosotros pedíamos que se emplease

que se emplee también independientemente del debate presupuestario que tendremos la semana que viene el gasto que el país gasta en las delegaciones vascas en el exterior la cooperación al desarrollo ese era nuestra enmienda de totalidad está bien claro

esa actuación exterior de nuestra comunidad autónoma veíamos mucho más interesante que esas partidas dedicadas las embajadas vascas en el exterior

podía formar parte de un interesante esfuerzo

presupuestario y sumar ese esfuerzo presupuestario de la reducción

al que podíamos pedir en nuestras enmiendas del presupuesto dos mil catorce del acuerdo al que usted ha aludido de veinte de junio de dos mil trece ahí se desprende un importante mandato efectivamente al que seguiremos haciendo seguimiento

no nos gusta la situación en la que estamos hoy pero vuelvo a decir que no va a ser un elemento de confrontación

que el gobierno asuma y practique y ese mandato es el punto número cuatro de aquella proposición

en el parlamento y que se aprobó el parlamento vasco insta al gobierno vasco a pactar con las coordinadoras

de cooperación al desarrollo adecuada a los recursos disponibles a las áreas en las que se ha

eso nos parece muy importante nos parece muy importante el hecho de que el gobierno acuerde el hecho de que el gobierno se acerque a las

organizaciones no gubernamentales a que hable con ellas a que exponga sus dificultades pero también a que acuerde a que concierte

que nos propone la mayoría presupuestaria en este momento

va a salir aprobada nos vamos a abstener nos hubiese gustado que se hubiese completado con ese punto cuatro

al que yo me hacía referencia antes el que se completaría con el tema de ese acuerdo ese pacto con la coordinadora

que nos daría las claves de que la cuestión a pesar de las dificultades está encauzada en esas claves de diálogo de acuerdo de acercamiento de posturas pero vuelvo a decir queremos ver cómo reacciona el gobierno

y efectivamente pediremos responsabilidades si no es así al principio
del siguiente periodo de sesiones eskerrik asko barrio jauna mistoa upyd

sí gracias presidenta nosotros no hemos cambiado de opinión como otros defendemos lo mismo que hemos venido defendiendo todos estos

seguimos defendiendo lo que votamos el día veinte de junio de dos mil trece pensamos que son importantes los cuatro puntos que este parlamento votó y aprobó hace unos meses nos parece un asunto importante no solamente haremos seguimiento en relación a lo que hace el gobierno en próximas fechas en próximos meses o en próximos años hemos hecho ya un seguimiento de qué es lo que ha hechos

criticado de manera contundente porque efectivamente ha habido recortes en el ámbito de la cooperación

rechazado de manera contundente y que están también recogidos para el próximo ejercicio dos mil catorce compartimos por lo tanto lo que

que el parlamento vasco se reafirma en su compromiso de solidaridad plasmado en la ley vasca de cooperación y expresa su voluntad de alcanzar el objetivo del cero coma siete por ciento del presupuesto anual destinado al programas de ayuda al desarrollo

insta al gobierno vasco a que en la ejecución presupuestaria del año dos mil trece mantenga un gasto equivalente al menos al cinco por ciento del total

a cooperación al desarrollo que este parlamento insta al gobierno vasco a que en los próximos proyectos presupuestarios preserve la proporción de gasto en ayuda al desarrollo alcanzada

adecuada a los recursos disponibles a las áreas en las que se ha concentrado la ayuda a lo largo de los últimos años y en los ejes estratégicos de intervención con el objetivo de mantener en materia de desarrollo la cooperación al desarrollo es una política fundamental en nuestra opinión en la agenda pública no es un tema menor en ella se expresan los contenidos más diversos de los derechos humanos la igualdad en todas sus vertientes la democratización la equidad la convivencia la justicia social y la lucha contra le exclusión social no podemos construir una sociedad avanzada

más justa e igualitaria la sociedad vasca no puede salir y no debería salir de la crisis renunciando a una política de la que siempre ha hecho gala y de la que nos sentimos orgullosos y que ha presentado y ha situado a euskadi

absolutamente necesario si en algunas cuestiones no lo hemos conseguido

el esfuerzo de seguir siendo referentes en la solidaridad internacional porque ahí es cierto euskadi lo ha hecho bien y es justo reconocerlo de ahí nuestra enmienda de totalidad aunque podíamos no haber presentado ninguna puesto que ya digo que

son los mismos que los que defendimos el veinte de junio de este mismo año en todo caso proponíamos instar al gobierno a mantener en los presupuestos de dos mil catorce el porcentaje destinado

a cooperación para el desarrollo y a definir una ruta temporal para llegar al cero coma siete por ciento del gasto total consignado en los presupuestos generales de la comunidad autónoma del país vasco tal y como se recoge en la propia ley de cooperación al desarrollo la cooperación ha sido un referente como decía a nivel nacional de sus veinticinco años de existencia no solo por la cantidad de fondos destinados que también sino por la evolución

casi siempre o siempre pioneros respecto a otras comunidades autónomas españolas la existencia de líneas de financiación tanto desde el gobierno vasco como de las diputaciones y de la práctica totalidad de ayuntamientos ha dado como resultado un tejido asociativo amplio muy vivo y donde trabaja un gran número de ciudadanos vascos involucrados en ellas nos parece esto ciertamente interesante en fin lo mismo por lo tanto que hemos venido defendiendo todos estos meses todos estos años

lo que siempre hemos defendido a diferencia del partido socialista lo cierto es que el partido socialista de euskadi según señala en su página web

parece ser que ha presentado una enmienda parcial al proyecto de presupuestos con la que solicita un incremento de quinientos mil euros para la cooperación internacional y ciento ochenta mil euros de apoyo a los saharauis algo que es a todas luces

y contradictorio por otro lado con la enmienda que había presentado para este debate y con lo que ha venido defendiendo en los últimos meses bueno cada uno sabrá qué es lo que firma

cada uno tendrá sus propios argumentos y en todo caso nosotros defendemos los mismos que hemos defendido antes siempre nosotros sí hemos presentado una enmienda parcial

al proyecto de presupuestos para que se incremente lo destinado a cooperación

por la mayoría de esta cámara creo que es justo y necesario seguir insistiendo en que este

ciertamente importante creo que la cooperación internacional debería estar al margen lo máximo posible de las estrecheces económicas en las que nos encontramos y si nos encontramos en

es impulsar políticas diferentes a las aplicadas hasta ahora para no tener que estar sufriendo

económicas creo que la cooperación internacional se lo merece creo que es un asunto de justicia social de solidaridad de igualdad de lucha contra la pobreza

que al menos hayamos podido volver a debatir este asunto y hayamos podido nosotros volver a defender las ideas que hemos defendido durante todos estos meses gracias

legebiltzarkideok arratsalde on guztioi yo no voy a admitir que usted me dé clases ni yo ni nadie de mi grupo

la historia del partido socialista se está construyendo desde hace muchos años más de cien años en este país

nosotros lo que sí hacemos es defender pero también tenemos la convicción

es aquello que se plasma en el boletín oficial en este caso en el boletín oficial del país vasco y que eso es lo importante por lo tanto

porque lo seguimos haciendo pero en este momento el partido socialista

a parte de que eso es importante también es importante aportar a esta comunidad autónoma novecientos millónes de euros para que se destinen a políticas sociales

la educación a mantener la sanidad y a mantener los servicios que se prestan en nuestra comunidad autónoma

consideramos que es importante que es muy importante también es muy importante la cooperación y al boletín oficial del estado va a ir menor de la que nosotros quisiéramos mucho menos de la que nosotros quisiéramos pero va a ir esa partida y algunas otras cuestiones que yo voy a tratar de explicarle que me imagino que no lo entenderá o que no querrá escuchar los

pero que en cualquier caso yo voy a seguir defendiendo la postura del partido

del partido de los socialistas vascos porque es la idea que nos va a seguir manteniendo a lo largo de toda esta legislatura lo mismo en este año pasado hemos defendido las cuestiones de cooperación como elemento fundamental de nuestra política de oposición hemos hecho una política de oposición y en estos momentos vamos a seguir en una política de oposición pero como le decía

compaginándola con la política de permitir que este país tenga unos nuevos presupuestos unos presupuestos que como decía favorezcan las políticas sociales y el estado de bienestar los socialistas

y eso es indudable porque además creemos que no podemos relajar la solidaridad internacional cuando los propios ciudadanos las propias ciudadanas vascas mantienen todavía esos niveles de solidaridad haciendo lo que pueden desde sus economías particulares como le digo nosotros les digo a todos

al propio partido nacionalista y al lehendakari del gobierno vasco seguimos defendiendo que

en los presupuestos de este año no se ha conseguido por qué no porque el partido socialista no lo haya planteado en más de una ocasión

con el partido nacionalista no por eso sino porque ustedes han hecho oídos sordos

del partido socialista para incorporar la cooperación en los términos que nosotros consideramos que es oportuno

porque ya se lo hemos comunicado a las ongs directamente nosotros no nos escondemos

las dificultades que nos hemos encontrado y cuál iba a ser nuestra postura nosotros hemos querido ser leales y claros

decir con claridad las circunstancias que se estaban dando y lo que nosotros habíamos tratado de alcanzar que ha sido imposible nosotros hemos denunciado y vamos a seguir haciéndolo la política de cooperación

desde el punto de vista de los criterios porque consideramos como ya le dije al lehendakari hace unas semanas que no encontramos criterios certeros de cara a la cooperación y el ejemplo más claro ha sido la incapacidad de responder ante

nosotros no hemos hecho estas cuentas nosotros hemos querido aportar los socialistas hemos aportado

las cuentas del partido socialista y esto lo saben ustedes y usted también lo sabe señor lehendakari y lo saben todos los grupos de esta cámara no son los presupuestos del partido socialista señora urrea si los presupuestos hubieran sido los del partido socialista el cero coma cinco por ciento o quizás más podría estar

reflejado en esos presupuestos en cualquier caso nosotros

es que aparte de una cantidad

una cantidad que se incorpora o que se incorporará después de la votación de las enmiendas al presupuesto inicial aparte de esto nosotros creemos que estamos en línea de conseguir que el gobierno vasco

entre en la senda de considerar a la cooperación en la medida que corresponde

la cooperación como una política social más y para ello en la enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo nacionalistas vascos incorporamos algunas cuestiones que desde nuestro punto de vista son importantes una que haya un compromiso

la tendencia que se ha empezado en dos mil trece que se modifique esa tendencia y que esa tendencia vaya hacia lo que son los presupuestos del partido socialista conseguir el cero coma cinco por ciento o mejor dicho

el referente del presupuesto dos mil doce cuando el lehendakari era patxi lópez

para las políticas de cooperación y aparte de esto creo que no es desdeñable conseguir que en el ejercicio dos mil catorce al menos

la cantidad que va destinada a proyectos concretos la cantidad que va destinada a proyectos en terreno la cantidad que va a poder ser distribuida para que luego las

las ejecuten eso es pasar de doce millónes y medio en las convocatorias que se han hecho en dos mil trece

al menos a los veinticinco millónes que nosotros hemos requerido al partido nacionalista que firme en esta enmienda transaccional que hemos acordado eso no es baladí porque usted también señora urrea y todos los que tenemos alguna relación con la cooperación sabemos que para las organizaciones

lo importante es que se aprueben proyectos se pongan en marcha proyectos porque los proyectos como todos sabemos bien

también en la enmienda transaccional que hemos firmado con el grupo euzko abertzaleak hay otro elemento que consideramos que es importante

de que la convocatoria se haga en el primer trimestre que no se deje como se ha dejado en

para el segundo semestre que se haga una convocatoria rápida que se haga una convocatoria

para este año dos mil catorce con qué pueden contar primero van a contar con el doble de fondos que el año pasado para proyectos en terreno para lo importante

allí donde se necesita la cooperación a realizarla y también que esto se haga

reconozco que el partido socialista nos sentimos de alguna manera frustrados

pero reitero lo que he dicho al principio cuando vamos a un acuerdo es una cosa de dos

a veces hay que rebajar las cuestiones no los principios pero sí los objetivos inmediatos y en este caso el objetivo inmediato

creemos sinceramente que estamos poniendo el camino estamos poniendo las bases para que los objetivos los principios se consigan a medio plazo mucho más pronto que tarde

el director de la agencia vasca de cooperación en comparecencia ante la comisión dejó claro el compromiso histórico que el gobierno vasco mantiene con la cooperación al desarrollo

junio decía el parlamento vasco se reafirma

plasmado en la ley vasca de cooperación y expresa su voluntad de alcanzar el objetivo del cero coma siete por ciento del presupuesto anual destinado a programas de ayuda al desarrollo

hirugarrena puntuari dagokionez el parlamento vasco insta al gobierno vasco a que

décadas de forma que cuando las circunstancias económicas lo permitan se pueda continuar el camino hacia el objetivo fijado en la ley vasca de cooperación

berreskuratzea laugarrena puntuari dagokionez el parlamento vasco

una estrategia en materia de cooperación al desarrollo adecuada a los recursos disponibles a las áreas en las que se ha concentrado la ayuda

con el objetivo de mantener el impacto en materia de desarrollo aipatu nahi dugu koordinadoratik kanpo ere

baita la ley vasca de cooperación establece los mecanismos y órganos para la colaboración

regula de forma estable los cauces para el debate y toma de decisiones y

es el consejo rector de la agencia vasca de cooperación en el cual este parlamento participa por medio de dos representantes que son miembros del mismo

señora urrea siendo usted una de las representantes de este parlamento

y estando tan preocupada por la cooperación como pretende estarlo trayendo iniciativas en esta materia nos sorprende sobremanera que no haya acudido a ninguna de las convocatorias del citado órgano urrea andrea hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da

señora urrea los jueves has ido dos veces se ha celebrado miércoles ayer y en lunes en martes no sé si ha podido o no pero no ha acudido el punto tres de la transaccional

pedía mantener para este año dos mil trece para la cooperación al desarrollo como mínimo

ya les dijimos y hoy reiteramos que es imposible porque lo que este gobierno no va a hacer es gastar más de lo que tiene o pueda pagar ni hipotecar ejercicios posteriores no todos los grupos pueden decir lo mismo tanto el gobierno como el partido que lo sustenta

durante todo este tiempo hemos manifestado nuestro compromiso firme con la cooperación al desarrollo descentralizada tanto en privado como en público y nuestra voluntad de volver a las magnitudes del año dos mil doce

sin renunciar al cero coma siete por ciento además de no renunciar nos comprometemos a trabajar para alcanzar el cero coma siete por ciento para cooperación al desarrollo porque es una exigencia legal

porque es de justicia social por otro lado hitzetatik ekintzetara pasatu behar dugula esaten digute askotan eh bilduko ordezkariek

eta horrela planteatu dugu agentziako kontseilu errektorean se han presentado y consensuado en el consejo rector de la agencia vasca de cooperación

reitero las orientaciones generales de la planificación estratégica plurianual dos mil catorce dos mil diecisiete con un calendario anual y cantidades concretas a destinar para cooperación al desarrollo en cada anualidad lehenengo txanda amaitzeko

rechazamos rotundamente este presupuesto por las consecuencias anteriormente descritas considerando además que las instituciones vascas tienen que ser un referente

con identidad transformadora esto implica una cooperación comprometida con el desarrollo humano es decir una cooperación cuyo objetivo sea la ampliación de las libertades derechos y capacidades de las personas y pueblos para una existencia digna basada en la ciudadanía universal y en la corresponsabilidad global orientada a la erradicación de la pobreza e incidiendo sobre sus causas estructurales sociales políticas económicas ambientales de género que evite el mero existencialismo y volcada en el acompañamiento de los sujetos de trasformación

afirmando por tanto que la cooperación debe acercarse muchísimo más a los movimientos sociales a acompañar los procesos de cambio de países verdaderamente comprometidos con la transformación social

a nuestro juicio las instituciones vascas deben evitar las nuevas tendencias de cooperación que tienen que ver con la privatización y la corporativización de la cooperación de la mano del papel creciente de las empresas transnacionales ya que se está construyendo una nueva lógica de cooperación basada en las alianzas público privadas en el que las instituciones públicas las empresas transnacionales y las ongds trabajan conjuntamente

y en las necesidades básicas asistenciales toda labor de incidencia política empoderamiento y derechos humanos puede verse perjudicada por esta nueva etapa de la cooperación y por tanto la cooperación vasca debe rechazar

la igualdad el internacionalismo la cooperación es evidente que pesan

en el balance de resultados de su partido cuando sacrifican su posición anterior de establecer unos recursos mínimamente decentes para la cooperación al desarrollo

por el de los acuerdos de país pero le preguntamos qué tipo de país

a aquello que decía el che que por cierto ha estado usted recientemente visitando su tierra que la solidaridad es la ternura de los pueblos y alejándolo a la cola de su prioridad de la acción política

el día adecuado para trasladarnos su prosa roja una prosa que seriamente se ve cuestionada hoy con la actitud que ha tenido ante este tema

como excusa cuando por ejemplo están tirando

cientos de millónes en un tren que no va a ninguna parte y que además

la macro infraestructura frente a las necesidades básicas de las personas

con un fragmento de la asamblea de trabajadoras y trabajadores del sector de la cooperación al desarrollo dice así el dinero que se destina a las partidas de cooperación al desarrollo

ciudadana y de compromiso con la justicia social y el bien común globalizado poniendo la crisis como excusa se está tratando de limitar y eliminar la solidaridad internacional

en la práctica estas decisiones están suponiendo un deterioro para el avance del desarrollo humano equitativo y sostenible incidiendo en las condiciones de vida de miles de personas

olvidamos las razones que hacen que esos países hoy estén más empobrecidos olvidamos que nuestros hábitos de consumo tienen incidencia directa en su situación olvidamos nuestro papel en el deterioro ambiental de su entorno olvidamos la deuda ecológica que tenemos con los países del sur

olvidamos que nuestras empresas especulan con los alimentos más básicos buscando inversiones más rentables en definitiva olvidamos que nuestro modelo de desarrollo es responsable directo de la situación de vulnerabilidad de las personas empobrecidas

desde el escaño

no es un tema ni de internacionalismo ni de ser de izquierdas ni de derechas es un tema de

la cooperación al desarrollo de las instituciones vascas ha sido ejemplar y debe seguir siendo la pelota está en el tejado del gobierno él debe de actuar ahora pero nosotros

reconocemos las dificultades que tiene pero vamos a dejar ese margen yo creo que

importantes no es un tema de ches no es un tema de fideles no es un tema más que de responsabilidad

estamos preocupados porque esta semana hemos estado reunidos con diferentes ongs y con la coordinadora y lo cierto es que

han trasladado su preocupación en relación con estas cuestiones yo creo que ahí es donde hay que poner la clave en ese punto cuatro al que me refería antes tiene que haber más

con todo ese colectivo vamos a analizar cuáles son los pasos del gobierno en ese sentido desde luego lo que queremos señor lehendakari y señores de la mayoría

hagan algo en breve muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

le decía antes señora urrea que hemos hecho lo posible hemos preferido

y no me han dolido prendas en reconocerlo antes y lo reconozco ahora

y además objetivos que no renunciamos a ellos no renunciamos a mejorar

en el presupuesto de este año como ya le he dicho en la propia enmienda transaccional

que desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo mejoran la propuesta inicial por lo tanto no renunciamos a mejorar lo que hay

fiscales más ambiciosas hemos procurado o hemos logrado la reforma posible en un momento para que se aplique porque como le he dicho yo antes señora urrea los socialistas procuramos

se plasmen en leyes se plasmen en el boletín se plasmen en algo contundente que no se queden en discursos tenemos discurso todo el que quiera todo el que quiera mejor discurso posiblemente que ningún otro pero nosotros aparte del discurso lo que queremos es plasmarlo

en esa dirección por eso vamos a exigir al gobierno que la

y también haremos un seguimiento de los presupuestos para que si se prevén mayores ingresos

de que estas partidas se incrementen ese es nuestro objetivo insisto

habla de todo esto el otro día hablando de esto lo posible

en la comisión de derechos humanos compadeció una compañera alcaldesa

yo le pregunte a esa compañera sobre la ley del aborto en aquel país sobre un país

un país en el que hay veintidós personas veintidós mujeres condenadas por haber abortado y en algunos casos sin estar del todo claro

o eran fortuitos no le vi a usted en aquel momento y a yo tampoco

y haberle dicho a aquella compañera de que cómo un gobierno

todavía podía encarcelar a mujeres por el aborto eso también es igualdad y también eso es cuestión de solidaridad

lo posible es lo que queda lo posible es

plasmar para siempre pero no renunciamos por supuesto a lo deseable muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

mire señora urrea lo que a nuestro juicio no tiene justificación es que usted no haya acudido a ni una sola reunión del consejo rector de la agencia vasca de cooperación no tiene

se hablaba le preguntaba al señor unzalu que qué país de qué país hablaba que país quiere se ha hablado del che del frente farabundo martí nosotros lo que tenemos claro es que lo que no queremos es eso ese tipo de países como puede ser venezuela al que ustedes miran en más de una ocasión

en el cual del año dos mil doce al año dos mil trece se han incrementado los gastos militares en un cuarenta y dos por ciento en los presupuestos le voy a dar un par de datos

un ciento treinta y dos por ciento es el gasto para gastos militares estamos hablando

por lo tanto y se lo han dicho otros representantes no nos hable de izquierdas ni de derechas lo que está claro es el compromiso claro del partido nacionalista vasco con la cooperación al desarrollo que estaba más que maduro antes de que

de iniciativas como la que hoy ha defendido decía en su primera intervención se planteaba que qué sentido tiene la discusiones que aquí mantenemos y nosotros nos planteamos qué sentido tiene representar

no acudir a las mismas por último

en tema de presupuestos pero creo que es fácilmente entendible

en este caso el gobierno vasco tiene una encomienda gestión se le da cien

un bolígrafo no se lo puede gastar en un balón o en un coche para el scalextric por lo tanto

al tav no tiene ningún sentido ningún rigor ni ninguna sentido respecto al partido popular le agradecemos su tono estamos de acuerdo que no es para confrontar que la cooperación al desarrollo lo que necesita es remando en la misma dirección y volver a la senda de por lo menos las cantidades que ya habían sido aprobadas en el año dos mil doce y ese es el compromiso firme de este gobierno de la agencia vasca de cooperación

y insisto sin renunciar al cero coma siete por ciento porque es

ley y además es de justicia social al representante de upyd la verdad que lo que hay que agradecerle señor maneiro es que usted es coherente y es el que ha mantenido junto al partido nacionalista vasco la misma postura que

en junio en el debate anterior también lo ha hecho euskal herria bildu me alegra

ha hecho bien las cosas en cooperación al desarrollo menos mal que alguna vez

que el estado en cuanto al partido socialista

defender aquí voy a ser benevolente con usted y solamente le voy a decir una cosa a nosotras también nos hubiera gustado que dicha cantidad para cooperación al desarrollo fuera superior y en aras a los acuerdos todo está muy bien pero usted sabe la cantidad que había para acordar

y el resto de la cantidad que había para negociar para otras cuestiones eso es así y simplemente insistir y reiterar